sí señor lehendakari el secretario de paz y convivencia del gobierno vasco ha presentado

que recoge una veintena de medidas relacionadas con la política penitenciaria que se aplica a los presos de la organización terrorista eta entre ellas figuran el acercamiento de estos reclusos a las cárceles vascas la puesta en libertad condicional de los mayores de setenta años el cómputo de penas cumplido en cárceles extranjeras la transferencia de la competencia de prisiones a el agrupamiento de los terroristas dentro de la misma cárcel reformar leyes como la de enjuiciamiento criminal para suprimir la detención incomunicada o reducir la prisión provisional aplicar medidas en investigación prevención y reparación

íntegro de las condenas entre otras ya digo que estamos hablando de una veintena de medidas planteadas a través de este programa por el señor jonan fernández

ni ha entregado las armas ni ha pedido perdón por los cientos de atentados crímenes y estragos cometidos durante cincuenta años

los requisitos que marca la ley para poder acogerse a los beneficios penitenciarios en concreto

para ayudar a resolver los crímenes cometidos por eta pendientes de esclarecimiento de lo que hablábamos en el punto anterior en nuestra opinión el gobierno

con la presentación de este programa y se lo diré también muy claro señor lehendakari quiere o pretende dar la sensación de que no vivimos en una democracia

esta es la sensación que quiere dar el gobierno vasco y en concreto el señor jonan fernández cuando presenta este programa quiere trasladar la sensación de que no vivimos en un estado de derecho y que los derechos de los presos de eta están vulnerados esto es lo que pretende por lo tanto el gobierno vasco y el señor

el estado de derecho y tratar de vendernos la idea de que los presos de eta son víctimas yo le quiero recordar los principios absolutamente irrenunciables

justicia reparación que no haya ningún tipo de impunidad cumplimiento estricto de la legalidad vigente sin trampas ni manipulación

de las penas para los presos de eta también quiero recordarle el documento de bases principios rectores para un modelo de fin de eta sin impunidad

presentaron todos los colectivos de víctimas del terrorismo no algunos sino todos el día veintitrés de noviembre de dos mil diez presentaron este documento de bases que sería interesante que el señor jonan fernández tuviera siempre

y en este informe en este documento se dicen cosas muy interesantes a tener en cuenta se decía en aquel momento que la debilidad de la banda no es fruto de la casualidad si no de la actuación decidida del estado de derecho en la lucha antiterrorista de los acuerdos entre los partidos democráticos de la colaboración y del hastío mayoritario con la violencia en euskadi y navarra así como el compromiso decidido del resto de españa en consecuencia es fruto de las políticas de tolerancia cero

puestas en marcha por los distintos gobiernos durante un determinado momento y ahí se anuncian también se plantean los principios rectores del modelo del fin de eta y se habla de la apuesta por la claridad la franqueza y se habla también de la apuesta por la sensibilidad con las víctimas del terrorismo y se apuntan unas notas básicas de un modelo de fin de eta sin impunidad y se dice que nuestra sociedad no debería olvidar que en un estado de derecho el derecho a la justicia real no es negociable ni y que si se permite algún tipo de impunidad muchas de las víctimas no podrán completar su duelo y que resulta necesario un modelo de fin del terrorismo con ley y justicia y se apuntaban ahí estos principios no a la impunidad en el discurso o evitar la impunidad los asesinatos de eta y toda su historia de acoso y coacción para la consecución de su proyecto político poseen más allá de la dimensión del daño causado una dimensión pública

por no privatizar el daño por no esconder la dimensión pública de lo que en las personas asesinadas quisieron destruir lo primero que se debe exigir a eta

de eta de no hacerse así uno de sus objetivos clave para el futuro será seguir utilizando su depurada capacidad propagandística para establecer que esa historia del terror ha sido una historia legítima y volverán a ofender gravemente a tantas familias rotas han provocado si los responsables del daño causado no asumen su responsabilidad y no denuncian la historia del terror pretenderán relativizar nuestra memoria y verdad como si fuera una opción más es preciso dice este informe tener muy claro

significa tanto como justificar cada uno de los asesinatos que componen esa historia de terror se apunta también otro principio fundamental como es el compromiso contra la impunidad jurídica y la tolerancia cero con las

asesinas y se reclama una política penitenciaria que no se convierta en una política de gracia y se dice que una política penitenciaria que llegara a basarse en la excarcelación anticipada de presos juzgados y sentenciados

en una aplicación laxa de la progresión de grados supondría una forma de impunidad y se reclamaba también el principio de cumplimiento íntegro de las penas y de la ley defiende también el principio de contra la banalización del mal en la comunicación en fin un documento de bases que recogen los principios rectores para un modelo de fin de eta sin impunidad este

a este parlamento y lo cierto es que este parlamento aprobó una iniciativa parlamentaria en la que se valoraba positivamente este documento

y se decía que este parlamento en la pasada legislatura comparte que las víctimas del terrorismo tienen derecho a la verdad a la dignidad a la justicia y a la memoria y coincide

en nuestro estado de derecho y en este sentido participa igualmente del rechazo que expresa a la

en fin es importante señalar también que es lo qué dice la ley en relación a todas estas cuestiones y los requisitos establecidos perfectamente en la ley para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario que ya digo que están en la ley y conviene también señalar cuáles son los requisitos establecidos en la ley para

condicional estar clasificado en tercer grado penitenciario

y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de

y según establece el código penal se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista

para la identificación captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas porque efectivamente la muestra definitiva de que un preso está arrepentido de que su petición de perdón si se produce no es falsa y de que está reinsertado o puede reinsertarse en la sociedad es su colaboración con la justicia

el artículo setenta y dos punto seis de la ley general penitenciaria señala que la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo

requerirá además de los requisitos previstos por el código penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonios presentes y futuros en los términos

que muestren signos inequívocos de haber abandonado a los fines y los medios terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades para ayudar a resolver los crímenes cometidos por eta por tanto para el acceso al tercer grado o la libertad condicional nuestra legislación exige la colaboración

en fin creo que nuestra ley la ley vigente es lo suficientemente clara y por lo tanto nosotros planteamos que se respete exactamente lo que dice la ley y que no haya por lo tanto ningún tipo de impunidad también es claro lo que dice el tribunal constitucional y lo que dice el tribunal supremo en relación

y cuando dice también que la reeducación o reinserción no es el único fin de la pena sino que esta ha de armonizarse con la exigencia de justicia y con otros principios en fin nosotros lo que queremos reivindicar en todo caso es el cumplimiento estricto de la ley y que no haya ningún tipo de impunidad que es lo que parece defender
en bastantes ocasiones el señor jonan fernández eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro pregunta usted en su interpelación por los propósitos que animan al gobierno en relación con la puesta en marcha del programa zuzen bidean al que ha hecho

sobre los que descansa esta propuesta que creo yo que son perfectamente compatibles con los principios de memoria verdad justicia y reparación a los que usted ha hecho referencia y que por supuesto

plantean o reivindican un escenario de impunidad todo lo contrario lo que plantean lo que preconizan es la vuelta el regreso una vez que puede

los principios básicos que inspiran el derecho penal y penitenciario con carácter universal que se han forzado que se han llegado a violentar en algunos casos en los términos que después expresaré en el contexto de la lucha antiterrorista como se expresa claramente en el cuadernillo

lo que se ha presentado por parte del gobierno por parte concretamente del secretario de paz y convivencia es un documento para el diálogo se trata por tanto de una

al debate no es una iniciativa acabada perfeccionada que haya de ser asumida necesariamente por el conjunto de la población sino una propuesta

abierto una normativa que pretende impulsar aquí en euskadi entre nosotros un debate una reflexión que ni es nueva

ni es original ni es tampoco y esto es importante subrayado específicamente vasca

es la necesidad de recomponer así dice literalmente el enunciado del cuadernillo la necesidad de recomponer tras el fin de eta

y penitenciario y efectivamente incluye veinte propuestas diez de las cuales preconizan una reforma del ordenamiento jurídico y las otras diez dan por supuesto que es posible una aplicación distinta del ordenamiento jurídico vigente en el ámbito penal y penitenciario

el documento arranca de un doble presupuesto el primer presupuesto es

algo creo yo que nadie iba a poner en cuestión en estos momentos hasta

lo ha venido a confirmar en reiteradas declaraciones esto podemos dar por hecho que es una realidad que ya no tiene vuelta atrás

independientemente el modo en el que tenga que solemnizarse y materializarse ese acontecimiento

y también permite abrir una reflexión en torno al contenido a lo que ha venido a representar la legislación penal

en el contexto de la lucha antiterrorista es el primer presupuesto del que arranca este documento y el segundo presupuesto del que arranca el documento es el de que en la lucha

se ha puesto en marcha durante los últimos treinta años un dispositivo legal en el ámbito penal sustantivo en el ámbito procesal penal y en el ámbito penitenciario que ha sido en muchos casos un dispositivo legal

de excepción y es bueno en un momento en el que se puede dar por finalizada la actividad terrorista de eta es bueno revisar la necesidad o reflexionar en torno a la necesidad o conveniencia de que esa excepción deba mantenerse o no

por qué es o ha sido en buena parte este dispositivo normativo este dispositivo legal por qué ha sido un dispositivo de excepción básicamente por dos motivos

ha supuesto en algunos casos un quebrantamiento de principios sólidos arraigados del ámbito del derecho penal y penitenciario

que no son ocurrencias venidas del cielo sino grandes conquistas democráticas fruto de más de dos siglos de lucha contra el absolutismo y su manera arcaica

con técnicas como la ley del talión con técnicas como el derecho a la venganza con técnicas como el derecho penal de autor que no castiga por lo que se hace sino por lo que se es

fruto de esta lucha secular en favor de las libertades y de los derechos fundamentales y contra las técnicas arcaicas

derecho penal sancionador del antiguo régimen surgen principios como el de legalidad penal con sus corolarios del principio de tipicidad y de proporcionalidad entre los delitos y las penas fruto de esta lucha democráticas surgen principios

como la presunción de inocencia como el derecho a un juicio justo como el derecho a la tutela judicial efectiva y todas sus manifestaciones

surgen también para el ámbito penitenciario principios como el del objetivo resocializador y reeducativo de la pena

cuando imperaba la ley del talión o el principio de que el penado

y sobre lo que el tribunal constitucional ha teorizado en repetidas ocasiones por tanto ha sido esta normativa

que son fruto de conquistas históricas alcanzadas después de luchas contra el absolutismo y

y en segundo lugar porque quiebra también en muchas ocasiones el principio de igualdad en la medida en que sin justificación aparente

en relación con actuaciones muy parecidas y muy similares reacciones o conductas medidas que son mucho más graves y onerosas

esta es una afirmación que no es que lo haga este gobierno no es que lo haga el secretario de paz y convivencia

la legalidad penal sustantiva procesal penal y penitenciaria dictada por el estado español durante los últimos treinta años ha incurrido en algunos excesos que no siempre han sido compatibles con los derechos fundamentales y libertades públicas no es algo insisto que lo diga este gobierno que lo diga este consejero o que lo diga el secretario de paz y convivencia no lo ha dicho el tribunal constitucional por ejemplo lo está diciendo el tribunal europeo de derechos humanos lo ha dicho la organización de las naciones unidas en repetidas ocasiones

en la conocida sentencia de veinte de julio de mil novecientos noventa y nueve cuando determinó por ejemplo que un

estaba mal configurado y era contrario al derecho fundamental a la proporcionalidad entre los delitos y las penas

cuyos miembros estaban integrados cuya composición resultaba de designaciones hechas por los mismos diputados y senadores que habían aprobado esa normativa de excepción lo llegó a decir el tribunal europeo de derechos humanos con todas las resoluciones que ha dictado recientemente a propósito de la doctrina parot

a propósito de la falta de investigaciones en relación con las denuncias de torturas y con las que probablemente dictará en relación con la posible vulneración del derecho a la vida familiar como consecuencia de la política de dispersión o de alejamiento una línea jurisprudencial que está empezando ya a marcar está claro ha puntado en esta misma dirección y lo ha dicho la onu el relator de los derechos humanos

pues se dan unos espacios para la incomunicación que facilitan enormemente las prácticas

lo dice es más es que todas estas prácticas y esta legislación procesal penal arranca de una previsión la recogida en el artículo cincuenta y cinco punto dos de la constitución que cuando se aprobó

del absolutismo en un texto constitucional democrático todo esto está ocurriendo estas reflexiones no son nuevas se han producido en euskadi en muchas ocasiones pero es que fuera de euskadi en los ámbitos penales entre los especialistas del ámbito penal y penitenciario están siendo objeto de un análisis

unas jornadas de derecho penal penitenciario y criminológico que tuvieron lugar en castellón

año y medio aproximadamente que están recogidas las actas en un libro publicado hace un año el nuevo panorama del terrorismo en españa donde alguien tan poco sospechoso como javier zaragoza fiscal jefe de la audiencia nacional

tachándolos de posiblemente inconstitucionales eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

sí gracias señor consejero efectivamente habla usted otra vez de recomponer

penal y penitenciario habla de dispositivo legal de excepción habla de quebrantamiento de principios sólidos habla de quebrantamiento del principio de igualdad habla de venganza habla

ninguno de estos calificativos para definir cuál ha sido la actuación de los poderes públicos en españa durante décadas en su lucha pertinente

contra la banda terrorista eta no lo aceptamos en absoluto y efectivamente

y de sus palabras se evidencia nuevamente que en última instancia lo que se pretende es tratar de vendernos la idea de que en españa

democracia y se han venido vulnerando los derechos de los presos de eta de manera permanente y esto es algo absolutamente falso que no estamos dispuestos

falso y nos parece absolutamente inaceptable que usted pueda lanzar esas acusaciones

las mejores leyes posibles para tratar de acabar con el terrorismo de eta se ha buscado hacer justicia a las víctimas del terrorismo y se ha tratado de

humanos de todos los ciudadanos eso es lo que se ha venido haciendo en españa durante los últimos treinta y cinco años por lo tanto no aceptamos esos calificativos que usted utiliza para definir la legalidad española en absoluto hay muchas medidas de las que hablar pero yo

plantea el acercamiento de los presos a prisiones cercanas a su domicilio pero es que esto hay que volver a recordarle a usted y a su gobierno que no es un derecho en absoluto el acercamiento no es un derecho de los presos según reiteradas sentencias judiciales señor consejero no es lo mismo un criterio orientativo que un mandato

beneficio penitenciario habrán de ser solicitados de manera individual y no es un derecho de los presos y de la misma forma cuando se habla aquí

no sé qué es exactamente lo que se está planteando los requisitos son claros lógicos y perfectamente razonables entre ellos con la justicia por parte de los presos de eta y si no se cumplen estos requisitos que son perfectamente democráticos y razonables lo que se plantea es que no pueda accederse a beneficios penitenciarios cosa que por cierto no se ha cumplido ha habido presos de eta que han accedido a beneficios penitenciarios sin cumplir estrictamente cada uno de estos requisitos

también y se plantea aplicar medidas legales en el caso de presos condenados por actividades antes ilegalizadas y ahora normalizadas planteando otra vez el excarcelamiento de arnaldo otegi no lo aceptamos

en absoluto o cuando se habla de la eliminación de límites interpretativos difusos en las garantías de protección que precisa el derecho fundamental

de expresión con lo que se propone nada más y nada menos que

dejen de ser delito esto usted lo defiende hoy aquí que la apología y la justificación del terrorismo deje de ser delito en fin observe también qué es lo que se ha hecho y qué es lo que está vigente en otros países europeos como en alemania o francia nos parece un absoluto

estas medidas y sobre todo nos parece un disparate que se pretenda otra vez poner en cuestión el estado de derecho en españa como si no viviéramos

las víctimas de toda esta historia ustedes pretenden

los presos de eta son víctimas y sus derechos han sido vulnerados negamos la mayor negamos absolutamente esas palabras negamos absolutamente este programa y evidentemente seguiremos defendiendo que no haya ningún tipo de impunidad cumplimiento estricto de la ley

incluido el cumplimiento íntegro de las penas es la mejor manera de hacer justicia eskerrik asko maneiro jauna erkoreka jauna zurea da hitza

señor maneiro es inútil uno puede empeñarse en ponderar sus palabras en medir sus expresiones

de que no se le atribuya lo que no ha dicho y usted directamente me atribuye lo que no he dicho

de la ley de talión como la norma o como la regla que inspira o que identifica la política penitenciaria de este gobierno español yo no he hablado de esto por favor

de los principios unos principios por cierto que como

especializada en el ámbito penal y que fuera de euskadi se está compartiendo reflexiones que se están llevando a cabo en otras universidades por parte de especialistas

que están poniendo de manifiesto que en un momento como el actual cuando el fenómeno terrorista

del abandono por parte de eta las armas definitivo e irreversible

que está ya en la academia que está ya en los especialistas del derecho penal

planteamiento que yo no he defendido en esta cámara yo no he dicho que este no sea estado de derecho yo no he dicho nada de esto podría decir podríamos reflexionar sobre el particular si es de buena calidad o de mala calidad yo recuerdo de un líder nacionalista que dijo que la democracia española

y ahora lo dice todo el mundo todo el mundo lo dice ahora como lo dice podemos

la sacrosanta transición y los esquemas incuestionables del estado español y del fundamento constitucional

para acreditarlo usted lo que quiere decirme es que a su partido lo que le gusta es la legislación actual y la interpelación más estricta de la legislación actual

no es partidario de ninguna modificación bien vale es un criterio que se puede defender en fin yo no le voy a

lo que sí digo es lo que en este momento la comunidad jurídica ampliamente está defendiendo el dispositivo normativo que en españa se utilizó contra el terrorismo durante los últimos treinta años en el ámbito penal sustantivo

está salpicado de elementos de excepcionalidad que han generado situaciones no siempre compatibles con los derechos humanos y las libertades públicas pero es que no lo digo yo lo ha dicho el propio tribunal constitucional que usted ha citado en esta tribuna

el tribunal constitucional integrado por miembros designados por esos diputados esos senadores que aprobaron esa legislación de excepción lo dijo no lo digo yo lo está diciendo el tribunal europeo de derechos humanos el tribunal europeo de derechos humanos no le inspira una mínima confianza no le inspira una mínima credibilidad institucional es

de la cultura europea democrática en el ámbito de los derechos fundamentales

y lo ha venido a decir reiteradas veces el relator de los derechos humanos de las naciones unidas claro si fuera una ocurrencia de erkoreka que viene aquí y suelta un discurso que puede ser compartido o no pues yo podría comprender su reacción atribuyéndome cosas que no digo pero

en mi intervención de citar las fuentes para que nadie me pueda hacer lo que usted ha pretendido hacer después afortunadamente tenía derecho a réplica y he podido salir al paso de su pretensión de caricaturizarme que es lo que habitualmente hace usted con el gobierno usted tiene un esquema

y entonces lo que pretende es forzar las palabras de los miembros del gobierno para hacerlas encajar en el esquema caricaturizado que usted tiene del gobierno y reducir nuestros planteamientos al absurdo pero afortunadamente insisto

me reafirmo en lo dicho y reafirmo las referencias a todas estas instancias que acabo de citar el propio tribunal constitucional y tribunal europeo de derechos humanos que todavía no ha dicho todo lo que puede decir y probablemente va a decir

a la que usted se refiere en su interpelación el relator de los derechos humanos casi nadie en relación nada menos con la legislación procesal penal

sí muchas gracias presidenta le pregunto señor lehendakari por el balance que usted realiza en relación

que se han destinado a la promoción y al aprendizaje y uso del euskera en euskadi durante los últimos treinta años cuál es el balance que realiza en relación a este gasto que no parece que sea poca cosa lo cierto es que a través de los trabajos parlamentarios que

upyd hemos podido conocer finalmente esa cifra ese monumental esfuerzo presupuestario realizado por los ciudadanos vascos durante los últimos treinta años en la respuesta se nos decía son mil ochocientos setenta y cinco millónes de euros

al euskera entre el año mil novecientos ochenta y tres y el año dos mil doce teniendo en cuenta que han pasado ya dos años y que están los presupuestos del próximo ejercicio dos mil quince prácticamente aprobados estaríamos hablando de

al euskera en fin cuál es el balance que realiza son

de pesetas ese es el esfuerzo presupuestario que hemos realizado los ciudadanos vascos solamente teniendo en cuenta lo que ha destinado vasco en relación a esta cuestión porque en estas cifras no están incluidas las cantidades destinadas por parte de las diputaciones forales y por parte de los ayuntamientos creo que al menos merecemos todos se haga una reflexión en voz alta para que se nos explique cuál es el resultado de esta extraordinaria cantidad de dinero destinado

donde se acumulan y se amontonan los recortes sociales

la desigualdad y la falta de dinero público para atender las necesidades reales de los ciudadanos en fin esperamos su disertación gracias

un dato hemos conseguido que el setenta y cinco por ciento de la juventud de menos de veinticinco años sea bilingüe esta es la mejor garantía de futuro para el euskera
un idioma de todas y de todos eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

y que la ley tiene que cumplirse pero esto evidentemente el cumplimiento de la ley no exige que se hayan tenido que dedicar nada más y nada menos que dos mil cien millónes de euros en los últimos treinta y dos años es decir trescientos cincuenta mil millónes de pesetas

inferior y se podría haber cumplido la ley de la misma forma incluso haber obtenido

se hubiera aplicado una política lingüística distinta a la que se ha venido aplicando que ha sido caracterizada por la imposición y el exceso con lo cual en fin muchas dudas en relación al cumplimiento de los objetivos y desde luego nos parece que es una absoluta barbaridad el dinero que se ha destinado al euskera durante los últimos treinta años porque

de los recortes sociales que han tenido que sufrir miles de ciudadanos

reiterando permanentemente especialmente en los últimos años que no había dinero suficiente para políticas sociales para

sanidad sin embargo parece ser que todo lo que ha tenido que ver con el euskera ha estado al margen de cualquier tipo de

también la existencia de una crisis por lo tanto yo le planteo esto los miles de ciudadanos vascos que han tenido que sufrir recortes y recortes sociales como consecuencia de los millónes y millónes de euros que se han destinado al fomento del euskera yo también quiero preguntarle por lo tanto por esto

la falta de recursos por ejemplo en las ayudas de emergencia social en las ayudas a la conciliación

de que se han destinado en los últimos años pues prácticamente más de cien millónes de euros todos los años eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

mique gros i lladós soziolinguistak honelaxe dio el euskera en el comunidad autónoma de euskadi

uno de los que concita mayor unanimidad social más alta rapidez en la recuperación porcentual del idioma el conocimiento crece anualmente el cero coma cinco por ciento desde el ochenta y uno es una de las mejores situaciones entre las lenguas que se han recuperado en el mundo

para garantizar la igualdad de oportunidades contamos con unanimidad social salvo la suya

se han demostrado eficaces el conocimiento crece el euskera se recupera el euskera
de todas y de todos espero que también el suyo eskerrik asko lehendakari jauna

señor lehendakari quería preguntarle cómo justifica

al deporte profesional muchas gracias eskerrik asko

no hay entrega de dinero público al deporte profesional eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

señor lehendakari sí hay entrega de dinero público al deporte profesional y en concreto

para la construcción de sus respectivos campos de fútbol o para la realización de

puedo remitirme hay entrega de dinero público para la construcción de un campo de futbol en bilbao y hay entrega de dinero público para la realización

de anoeta y todo esto mientras los resultados de estos clubes de fútbol pues efectivamente gozan de muy buena salud lo décimos en nuestra justificación qué lo que ha ocurrido por ejemplo con el athletic de bilbao que traspasó a su jugador

por treinta y seis millónes de euros y al jugador también javi martínez al bayer de munich por cuarenta millónes de euros

el club de fútbol recoge estos ingresos lo cierto es que tenemos que seguir destinando dinero público para la construcción de un campo de fútbol que va a utilizar exclusivamente el athletic de bilbao y cosa parecida en lo que se refiere al campo

municipal que sea y ya digo a los hechos me remito lo cierto es que los datos están ahí y hemos podido conocer por cierto recientemente

con un superávit de veintiocho millónes de euros y tiene previsto en la presente temporada lograr un superávit de veintisiete millónes de euros más es decir

millónes de euros o el superávit también que se plantea en la real sociedad en relación a los próximos ejercicios superávit multimillónario

ciertamente lamentable que sigamos destinando ayudas públicas para la realización de determinadas obras que únicamente van a disfrutar

mientras se han venido recortando derechos sociales mientras se han venido impulsando o consolidando recortes sociales

que no hay dinero suficiente para atender las necesidades reales de los ciudadanos el gobierno se queja permanentemente de que no tiene ingresos

ciudadanos que están sufriendo la pobreza que están sufriendo la precariedad que están sufriendo la falta de recursos públicos y mientras tanto estamos financiando la actividad deportiva o la construcción de determinadas infraestructuras que solamente

pero hay muchísimas más estos son los hechos y a nosotros ciertamente nos parece que es absolutamente injusto gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro si usted pretende caricaturizar a este gobierno como antes se la he dicho es que

pleno de control tras pleno de control no se está caricaturizando usted a sí mismo resulta que viene aquí con las subvenciones a la real sociedad y al athletic de bilbao

o cuando nuestra aportación económica en el caso de la remodelación del complejo deportivo que utiliza o la infraestructura que utiliza la real sociedad es a otra sociedad que no es de la real sociedad

en el caso del athletic además creo recordar que son los órganos europeos

señor maneiro yo le pido que sea usted muy riguroso en sus intervenciones de la misma manera que pretendemos serlo todo el resto

tenemos una política de financiación del deporte a través de convocatorias públicas que responden a los principios de transparencia e igualdad y no discriminación financiamos programas de las federaciones deportivas

y la organización de competiciones de alto nivel y debería ser usted más riguroso ningún club de futbol ha recibido subvención alguna en esta legislatura

en cuanto a los equipos de baloncesto por citar otra modalidad deportiva masculinos y femeninos han recibido una cuantía

euros para la socialización y promoción del mundo basket

se otorgan atendiendo a criterios de contribución al interés general así como al ámbito económico social y deportivo y no son a las sociedades deportivas

la aportación del gobierno vasco para la remodelación del conjunto deportivo de anoeta señor maneiro permítame que se lo recuerde de la misma manera que usted pretende recordar a este gobierno todo lo que a usted le interesa permita que los demás le recordemos a usted también

y en ese caso solo obtuvo un voto favorable solo un voto favorable el suyo el club las instituciones los partidos políticos y la sociedad

como haciendo que yo reconozca que hemos aportado a la real sociedad cuando no es a la real sociedad señor maneiro sea usted riguroso sea usted riguroso

siempre piensa siempre piensa que solo usted está en lo cierto y el resto se equivoca

no es cierto y usted lo sabe porque se lo hemos dicho reiteradamente también por escrito el athletic de bilbao no ha recibido subvención la real sociedad no ha recibido subvención el euskaltel euskadi al que también usted

en su pregunta no ha recibido subvención le he vuelto a explicar cuál ha sido nuestra contribución a los clubs deportivos profesionales y lo cierto es que la realidad económica actual

por hoy quería preguntarle al gobierno si considera que nos encontramos ante un proyecto de presupuestos que atiende las necesidades reales de la ciudadanía gracias

meses o semanas lo que ha planteado es que este proyecto de presupuestos recoge determinados incrementos en relación al proyecto de presupuestos o a los presupuestos de dos mil catorce nosotros lo que proponemos es ampliar más la mirada y observar qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios en relación a la aprobación de los diferentes

creo que es una evidencia que en este proyecto de presupuestos que se va a aprobar en breve con el apoyo del grupo socialista se consolidan determinados recortes sociales

que se habían aplicado en los ejercicios anteriores por lo tanto yo le pido que haga una mirada más extensa en relación a los presupuestos de los últimos ejercicios para saber exactamente de dónde venimos

algunos datos para al menos hacerle reflexionar que yo creo que evidencia

viene diciendo en relación a la consolidación de recortes sociales nosotros pensamos que efectivamente se consolidan los recortes sociales impulsados durante los últimos ejercicios y se limita el estado del bienestar las cantidades destinadas a educación

mientras que en dos mil nueve suponían el cinco coma tres por ciento las cantidades destinadas a salud suponen el tres coma siete por ciento del pib mientras que en dos mil nueve suponían el cuatro coma tres por ciento

el suficiente esfuerzo presupuestario en materias que son absolutamente sensibles y primordiales para garantizar no ya el presente sino el futuro de la sociedad

becas innovación competitividad emprendimiento internacionalización

incrementos muy leves en relación a los últimos presupuestos si

es evidente que no estamos en disposición de afirmar estas cantidades suponen un incremento en relación a años anteriores las ayudas de emergencia social lo que se ha presupuestado en este proyecto de presupuestos no va a alcanzar la demanda que se va a producir con toda seguridad en el año dos mil quince no va a alcanzar

que va a ser insuficiente y cosa parecida en relación a las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar se presupuestan en algo menos de treinta millónes

insuficiente mientras se destina a la euskaldunización ciento quince millónes de euros o se destina a la e i te be

o mientras el gobierno se niega a impulsar todas esas reformas pendientes en euskadi

en fin ya digo hay miles de ciudadanos que van a sufrir este proyecto de presupuestos porque sus necesidades no son atendidas

me refiero se podría haber hecho mucho más para atender la situación de pobreza de desigualdad

en la que se encuentran miles de ciudadanos por eso nuestra conclusión es que este proyecto de presupuestos no responde a las necesidades reales de miles de ciudadanos vascos

muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios lehendakari

buenos días bueno estas semanas hemos asistido a una lo que tenemos que considerar noticias buenas

para lo artístico creo o a falta de saber los detalles porque

de estudiarlo y de la comparecencia que la señora consejera tendrá

en este parlamento en la comisión de cultura en relación con la aprobación del documento de renovación del acuerdo con la entre el museo guggemhein bilbao y la fundación salomon r guggemhein

el día tres de diciembre el lehendakari presidió el patronato

documento esa renovación del acuerdo el día

nueve según los medios de comunicación también ocurrió lo mismo en nueva york

el anclaje de lo que será una futura andadura

que desarrollar las capacidades del museo y muchas otras cosas y en esas

después de los trabajos de la ponencia y de haber asumido que la ponencia que estudió el museo guggemhein debía de profundizar en algunas cuestiones

pero sobre todo sobre el arte vasco sobre el arte vasco sobre la internacionalización a ver cómo mejorar la presencia del arte vasco en el museo guggemhein y a ver cómo mejorar a través de ese instrumento

creadores vascos en el ámbito internacional a

y nos gustaría que el máximo protagonista de lo que puede ser

barrio agradezco el tono de su intervención y el contenido de su intervención porque creo que es importante destacar que este nuevo acuerdo aporta mayor estabilidad

de bilbao que lo que tenía en el periodo que todavía está por cumplir hasta el día veinticuatro de este mismo mes de los veinte años pasados lo que hace veinte años era una incógnita ahora es una certeza y creo que es

a las instituciones vascas un acuerdo más equilibrado en la toma de decisiones así lo han considerado por unanimidad todos los miembros del patronato también del museo guggenheim yo sí le puedo asegurar que en lo que ha sido el proceso negociador

octubre del año pasado en que viajamos a nueva york entre otras cosas también para mantener una reunión con la fundación salomón guggenheim nueva york

las recomendaciones de la legislatura pasada de la ponencia de este parlamento vasco usted cita en su pregunta el punto número once de las

una pauta que vamos a llevar a efecto el nuevo acuerdo

además de las explicaciones que la propia consejera ofrecerá con todo lujo de detalles en la comparecencia solicitada el nuevo acuerdo garantiza una mayor interacción local global que es lo que dice la recomendación cinco se compromete con una colección de arte vasco contemporáneo

con una colección de arte vasco significativa y de calidad que es lo que dice la recomendación nueve con una programación de exposiciones temporales vinculadas con el país vasco

o con la mayor colaboración con las universidades vascas que es la recomendación catorce por no citar

participar cada año en nueva york como también el número de artistas vascos que puedan participar también en el intercambio con la fundación guggenheim nueva york

del efecto guggenheim tal como usted también ha reclamado que tenemos que seguir trabajándolo en los próximos años considero que es una oportunidad porque hasta la fecha ha repartido o ha reportado mejor dicho

en estos años ha reportado beneficios al arte vasco dentro y fuera de nuestras fronteras algo que hemos de profundizar y algo que insisto es la pauta también

por parte de la representación de las instituciones vascas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

gracias presidenta gracias lehendakari yo creo que es la clave

se ha construido una realidad en estos otros veinte en relación con el museo guggenheim con bilbao con su trayectoria con lo que pueda ser pero la signatura pendiente

la propia ponencia sobre la relación del museo guggenheim bilbao con el arte vasco y el contexto local

había dicho nos lo dijeron los expertos que había estado desconectado un museo

desconectado de la realidad local y eso es lo que hay que profundizar efectivamente

internacionalización del arte vasco como objetivo prioritario de los responsables no se ha desarrollado suficientemente en el museo

la potente red internacional guggenheim no parece que haya sido un vector suficiente para la proyección del mundo artístico y creativo vasco ahí están las asignaturas pendientes y por eso le preguntamos a usted y

porque es importante efectivamente otras claves dentro de las recomendaciones

de comprometerse a cumplir con la disposición acordada anteriormente de dotar una colección de arte vasco de que

y de reflejar un discurso genealógico y generacional del mismo hablaba

colaboración con las universidades tenemos facultad de bellas artes

es decir esa es la gran clave de los próximos veinte años una será seguir manteniendo la tensión artística internacional y desde luego en ese sentido esta es la primera etapa señor lehendakari la segunda será el chillida leku que es mil veces

años de experiencia de éxito en el guggenheim y veinte años de oportunidad por delante

insuficiente y que es una asignatura pendiente también para el arte y la cultura en euskadi y creo que ahora sinceramente podemos aspirar a más mire compartimos el objetivo

incluye un programa para que artistas vascos puedan intercambiar experiencias mejorar sus capacidades y ampliar sus estudios en nueva york incluye un compromiso para seguir ampliando la colección propia con especial atención a la obra vasca contemporánea incluye también la presencia de artistas vascos en las exposiciones a organizar

de la internacionalización del museo de bilbao creo que están sentadas las bases para lo que puedan ser un desarrollo en aras a estos objetivos en los próximos veinte años

este ámbito de negociación ha sido refrendado por unanimidad también teniendo en cuenta las recomendaciones planteadas por este parlamento eskerrik asko lehendakari jauna

eguerdi on me gustaría saber primeramente

responderá a la pregunta que

no estamos hablando usted hablaba antes y sobre todo le decía a un portavoz anterior que nos estábamos equivocando del área competencial todo lo contrario de lo que trataba mi pregunta y creo que ustedes los del gobierno se están equivocando del área competencial es de si van a dar amparo y cobijo político a un alto cargo político acusado de corrupción y eso

con lo cual quien me debería estar respondiendo quien debería responderme es el señor lehendakari por favor le pido que no me hable usted ni de que

una mejora en los servicios ni nada porque de lo que los pasivos con los que cuenta el señor

clientelismo político amiguismo pelotazo urbanístico

previos pagados por las empresas adjudicatarias amenazas y tráfico de influencias usted no tiene nada que contarme es el señor lehendakari que tristemente no me está prestando mucha atención el que me tiene que dar y decir si usted cobija y ampara

políticamente ustedes amparan y cobijan a un corrupto políticamente sí o no

sí o no señor lehendakari es bastante sencillo no quiero que me hablen de gestión

a usted directamente pero como siempre tendremos que ver cómo responde

nik ez dut esan que ustedes se equivoquen de área competencial

mezclando y confundiendo intencionadamente ámbitos institucionales diferentes además de momentos diferentes y además de cuestiones diferentes

a los órganos municipales del ayuntamiento de leioa abordar estas cuestiones en las instancias en los que entiendan oportunas nosotros nosotros como gobierno

y por cierto no nos ocupamos directamente del metro de bilbao formamos parte del consejo de administración de metro de bilbao y del consorcio de transporte de bizkaia pero no

no si nosotros y nosotras somos concientes de lo hacen ustedes y de lo que no están haciendo

es poner a esa persona fuera del cargo político que hoy ostenta porque lo que no ha dicho usted es que ustedes forman parte del consejo de dirección

con lo cual algo tendrán que decir también en esto y por eso le preguntábamos al señor lehendakari y no a usted porque de nada o

si gestiona mal si lo hace regular o lo hace peor que el anterior lo que queríamos saber es ustedes amparan a un corrupto

de alta dirección política sí o no y si es sí digan porque y si es no digan qué van a hacer al respeto y le vuelvo a preguntar señor lehendakari yo creo que simplemente con un gesto

a todos y a todas más tranquilo amparan y dan cobertura política

sí o no la comisión el ayuntamiento de leioa

todos todos menos ustedes diga diga ampara políticamente a eneko arruabarrena sí o no

sencillo ampara sí o no ampara las acciones que realizó como alcalde con el pelotazo urbanístico de cincuenta y tres millónes sí o no las obras de las piscinas sí o no dígalo dígalo

sí o no mesedez eskerrik asko lópez de munain

bai bueno ya sé que soy poca cosa para usted señor munain pero le voy a contestar yo ahora también y no me voy a erigir ni en juez ni en comisión unipersonal de investigación ni en nada parecido

porque soy firme defensora de la presunción de inocencia y yo no voy a poner

en cuestión de una manera tan demagógica como lo hace usted insisto hablamos siempre de la presunción de inocencia y de la gestión

y no le voy a aburrir pero le voy a repetir porque además hay más cosas de las que he dicho antes también le puedo decir que se ha adelgazado la estructura directiva

que el índice de cobertura de la sociedad alcanza ya el ochenta y cinco coma trece por ciento

de nuestro propio gobierno por tanto a nosotros que nos toca velar y cuidar dentro de los consejos de administración de metro bilbao de consorcio de transporte de bizkaia cosa que no eludo responsabilidad lo único que he querido dejar claro es la confusión

encima de la mesa entre gobierno consorcio de transporte de bizkaia metro bilbao etcétera

que usted quiere manifestar pero no eludimos la responsabilidad

y además estamos muy contentos de la labor que se está haciendo con esos organismos públicos eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera

sailburu jaun andreak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi la directora general y su equipo merecen nuestro respaldo mejores resultados con menores recursos es la ecuación de la buena gestión profesional y esto es lo que respalda este gobierno son palabras suyas señor urkullu del pasado catorce de noviembre zu izan zinen

arabera zuzendari nagusiari babesa ematea justifikatu zuena porque aunque admitió que tampoco los contenidos de nuestra televisión pública eran de su plena satisfacción

a la línea editorial como elementos claves para mejorar la gestión de e i te be usted auguró con una audiencia acumulada entre los cuatro canales de televisión del trece por ciento

pero lo peor no es eso lo peor es que durante todo este tiempo ustedes han mirado hacia otro lado pérdidas de audiencia mes a mes décima a décima así ha sido este año

el año en el que con este argumento y otro se pidió la dimisión de la directora general que sin embargo obtuvo el respaldo expreso

señor unzalu efectivamente el pasado catorce de noviembre en contestación a una pregunta del parlamentario señor maneiro creo recordar afirmé que e i te be cerraría este año con una audiencia del trece por ciento así lo dije y usted vuelve sobre el mismo tema un mes después lo que ocurre señor unzalu creo sinceramente es que los datos

y que usted los puede consultar y puede consultar la información de la única empresa de medición de audiencia en televisión de la única empresa y usted lo sabe bien kantar media comprobará que hoy e i te be cumple el objetivo de audiencia del trece por ciento

a los datos de audiencia de kantar media y comprobará cómo cumple con los datos de audiencia del trece por ciento sí señor unzalu

y hoy se encuentran en primera posición hoy a día doce de diciembre están en primera posición no entiendo por tanto a qué viene cuestionar lo incuestionable

doce por ciento menos y logra mantener sus resultados de audiencia en el trece por ciento y reitero como dije en su momento hace un mes

si sumamos los cuatro canales de televisión no llegamos al trece por ciento insisto estamos entorno al diez y es claro que etb

es tanto una cuestión de presupuesto como de voluntad política cuando el año pasado se fijó el presupuesto se fijó también que con él

y en este caso y en este sentido el fracaso de e i te be es manifiesto

alguien tendrá que rendir cuentas alguien tendrá que decir por qué y alguien tendrá que decir cómo se va a corregir y enderezar esto es

que tienen que hacer porque señor lehendakari es muy preocupante que estando en el ecuador de su legislatura no se haya hecho un análisis autocritico de lo que está pasando en el servicio público

el más mínimo análisis autocrítico usted como máximo responsable del ente debería hacer un análisis muy crítico de las razones de la huída de audiencia de por qué el público euskaldún

no sintoniza la única oferta de televisión en euskera el uno coma seis por ciento de la población vasca

por qué no se cumplen los objetivos que tienen marcados por ley el ente público eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan

y usted señor lehendakari deberá tomar la iniciativa y tomar medidas que desde nuestro punto de vista no son otros

una programación de calidad y una línea editorial acorde con lo que debe ser un ente público de comunicación le pedimos que lo haga señor lehendakari que usted mismo como máximo responsable de este gobierno tome medidas ya porque

puede ser cada día mayor e incluso puede llegar a ser irreversible

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor unzalu le pido que revise los datos de kantar media la empresa de medición de televisión no sé

o de quién pero manéjese con los datos de kantar media

son del trece por ciento he mostrado y reitero el respaldo del gobierno a la gestión profesional de e i te be y en cualquier caso e i te be

creo que es demostrado que su gestión es transparente usted también es miembro del consejo de administración de e i te be es también usted miembro de la comisión de seguimiento y control de e i te be

para plantear cuantas propuestas considere de interés para lograr una mejora del servicio público de radio y de televisión

para e i te be en estos foros yo no tengo ningún inconveniente en responder a todas las cuestiones que usted pueda plantear ahora bien convendrá conmigo en que

contribuye poco a consolidar unos medios de comunicación públicos y profesionales este es el objetivo central que como comunidad debemos preservar beraz asken finean

un museo que es un éxito para bilbao y para euskadi y precisamente por eso no debería tener que interpelarle hoy pero no tengo más remedio porque el oscurantismo

me obliga a reclamarle que envió usted a esta cámara sin más dilación el texto completo del acuerdo renovado que han firmado con esa fundación

reiteradamente a concretar en esta cámara de qué forma proponía incorporar al acuerdo las resoluciones de la ponencia parlamentaria respecto al guggenheim

hemos pedido explicaciones siempre sin obtener respuesta

en la que se exige intensamente transparencia a los poderes públicos

y del uso de ese dinero y no hay respuesta todavía hablamos también de si su gobierno cumple o no las decisiones de este parlamento porque he preguntado directamente a la consejera

renovado y si vamos a tener por fin capacidad para definir la configuración

con lo fácil que es decir sí o no o dar explicaciones más concretas se ha anunciado que se va a pagar un canon anual fijo de uno coma nueve millónes de euros aproximadamente pero no han especificado ustedes qué es lo que se paga exactamente con esta cantidad de forma que pueda comprobarse si la fórmula es más ventajosa o no

pues mire como este dinero es público también tiene que ser público

del gasto concreto que se le da en definitiva lehendakari

con un oscurantismo muy alejado de la transparencia obligada una transparencia que usted y su gobierno publican constantemente asunto no se ve y le aseguro que si el acuerdo responde a lo previsto en este parlamento yo se lo reconoceré por eso le pregunto

de las recomendaciones hechas por la ponencia de este parlamento eskerrik asko reyes jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea señor reyes las

de la ponencia parlamentaria han sido tomadas en consideración de cara a la firma del nuevo acuerdo con la fundación guggenheim resulta pertinente creo comenzar destacando la primera porque efectivamente tal y como se recomendaba nos encontramos ante un contrato que ha sido reconocido por todos los miembros del patronato por unanimidad más equilibrado en la toma de decisiones mire estuvimos en el proceso negociador y no voy a entrar en las expresiones

o de falta de transparencia salvo que pueda tener alguna aclaración posterior tomamos como referencia determinados principios para la renovación del acuerdo

actualizando los contenidos del mismo con el fin de reflejar las condiciones operativas actuales consolidar la participación de las administraciones vascas en los órganos que gobierne y de

guggenheim fundation profundizar en la colaboración dotándola de nuevos ámbitos y proyectos que aportaran un valor añadido a la misma reforzar la programación artística

salomon guggenheim fundation de los siglos veinte y veintiuno durante seis meses cada dos años

para terminar la gestión operativa incluir a la guggenheim bilbao museo

y becarios del país vasco en nueva york garantizar un nivel adecuado de aportaciones financieras de las administraciones vascas

en la negociación un proceso negociador que no puede ser en abierto como usted entenderá

en el nuevo acuerdo que establece una retribución tasada y única por todos los servicios de la fundación a diferencia de lo que anteriormente se pudiera

y se reconoce el criterio de economía de escala para las exposiciones compartidas no creo por lo tanto señor reyes que el oscurantismo y falta de transparencia sean los conceptos más adecuados

no puede ser en abierto y donde ha de tenerse en cuenta también insisto que ha sido suscrito con la unanimidad de los veintiocho miembros del patronato del museo tenga en cuenta también que el guggenheim bilbao cuenta con diecinueve medios de comunicación benefactores

asociadas la información sobre el acuerdo y la gestión del museo creo que hoy es pública es transparente y desde luego espero que en lo que pueda ser el detalle que se le pueda
ofrecer pueda usted también corroborar como usted bien ha apuntado el éxito en la negociación eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna reyes jauna zurea da hitza

en el parlamento no es un socio que aporta una ayuda en este parlamento una resolución formal y sí se cumplen se puede decir

respecto a esas cuestiones aprobadas por el parlamento o no y no se ha dicho es más cuando se ha hablado

no se ha llegado al acuerdo espero que llegue con urgencia para poder analizarlo tanto

respondieron según tres periódicos a la petición de información sobre el gasto con una actitud

los tres periódicos lo dicen los tres periódicos lo dicen y mire incumplimientos hay porque

para ver los cumplimientos que hay pero incumplimiento fundamental por ejemplo es que el señor bidarte

por la doble responsabilidad que tiene es un incumplimiento flagrante para hacer cumplir además las resoluciones de este parlamento y hay algo que es fundamental el futuro del museo la colección y no se hace tampoco por lo que dicen la contratación de un director artístico

la obra propia del museo y eso es el futuro no solo vasca sino internacional
qué pasa si la marca guggenheim desaparece o rompemos el acuerdo tenemos que eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor reyes respeto las interpretaciones que tres medios de comunicación hubieran podido hacer de las respuestas que ofrecimos a determinadas preguntas de los periodistas

una insistencia en lo que era el coste económico si era más barato si era más caro si era más barato que el anterior

era esta la insistencia a partir de ahí las interpretaciones de lo que pudieran ser

la persona delegada en lo que ha sido el proceso negociador ha sido otra persona que usted sabe que forma parte también hecho en lo que es el órgano de guggenheim nueva york como es el señor azua quien ha participado en representación también de las instituciones vascas yo creo que

los resultados son evidentes que este contrato es positivo para euskadi para el arte para la cultura vasca
para la proyección y para internacionalización de nuestro país esto es lo importante eskerrik asko lehendakari jauna

miembros del gobierno señor erkoreka en relación con su calidad de

hablando de lo que es un servicio esencial de la administración

esta pregunta es decir vimos como el parlamento vivió el otro día una el día cuatro de diciembre una situación insólita en relación con la suspensión de lo que así había sido una tradición

en relación con la recogida de sangre en la sede legislativa y eso fue como consecuencia de la huelga convocada en osakidetza es decir no fueron razones que podíamos ver

o clínicas o médicas sanitarias epidemiológicas de riesgo de alguna cuestión sino que fue

parlamentarios los medios de comunicación y la gente que estaba en el parlamento los funcionarios

una situación que desde nuestro grupo tenemos que calificar de gravísima la donación de sangre que lo conocemos bien parlamentarios y parlamentarias de esta cámara porque hemos visitado

en euskadi y además sabemos de la colaboración y de la solidaridad de los vascos en relación con esta cuestión la donación de sangre práctica y de necesidades es insustituible

y no puede verse afectada por una huelga sindical sobre condiciones laborales

humanas y lo ocurrido en el parlamento y suponemos que en otras instituciones y en otros ámbitos y en otros momentos o localidades en las unidades móviles

al que no nos debemos dejar exponer por eso preguntamos por qué el gobierno

como consecuencia de la huelga las jornadas de donación de sangre allí donde estaban convocadas el cuatro de diciembre

señor barrio voy a esperarme en darle una respuesta que solo afecta de manera tangencial

forzada porque se hace referencia a un organismo

la dicta otro consejero del gobierno pero bueno insisto

los servicios mínimos en relación con los organismos

a propósito de esa huelga en una orden de cuatro de noviembre del año dos mil catorce de este mismo año

por lo que se refiere a los servicios sanitarios decían que

debía ser el mismo de los días festivos

el responsable de la recogida de sangre los servicios mínimos se ubicaron todos en la sede central del servicio del centro vasco de transferencias que está ubicado en el hospital de galdakao que es el único que trabaja los trescientos sesenta y cinco días del año el cuatro de diciembre sorpresivamente el chófer responsable de la unidad

encargada del transporte se declaró en huelga anunció que iba a hacer huelga

había la posibilidad de forzar las cosas para encontrarle un sustituto pero con grave riesgo de que el gobierno fuera acusado de incumplir la orden de los servicios mínimos

de un derecho fundamental estamos hablando de un dilema que se planteaba en el ejercicio de un derecho fundamental

es una actividad muy importante de primer orden pero es algo dilatable es algo que puede retrasarse en el tiempo es decir la sangre que se puede recoger hoy se puede recoger

siempre y cuando los bancos de sangre estén perfectamente dotados como era la situación y en ese momento ante ese dilema

a pasar por el parlamento vasco a cumplir ese servicio el próximo mes de febrero que es el compromiso que ha asumido porque durante el mes de enero el parlamento

no tiene actividad ordinaria eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna barrio jauna

entiendo la respuesta pero pedimos al gobierno una

no puede ser que la sorpresa de un chófer inhabilite

aprendimos una lección importante el otro día quizá la hemos minusvalorado pero la aprendimos en el parlamento el otro día yo creo que

esa circunstancia no nos hizo ponernos en contacto con la asociación de donantes y vimos que no es la primera vez que pasa cuando hay huelga en personal sanitario y eso es grave es muy grave

sabemos lo que es efectivamente lo que los bancos de sangre hacen precisamente almacenar sangre

el trabajo día a día y además la percepción

esa circunstancia y que su incumplimiento puede generar alarma además no puede generar alarma la puede causar sabe usted que un servicio público es esencial que tiene que ver

muchas veces no pasan y que generalmente y afortunadamente no pasan isiltasuna mesedez accidente con catástrofes con grandes accidentes con operaciones con tratamientos de día a día

todo el entorno y lo sabemos además muy bien porque eso se fundamenta además en una

con los profesionales por un lado pero con la sociedad perfectamente implicada

ha sido una cuestión muy grave desde nuestro punto de vista y que sirva esto de toque para el futuro muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señor barrio seguramente ha planteado una cuestión usted

esenciales que son los que se tienen que garantizar con los servicios mínimos se incorporan

le puedo decir que el stock de seguridad de los bancos de sangre del centro vasco de transfusiones

no puede hablarse de una alarma social dado que no existe riesgo alguno al respecto puesto que las necesidades del centro se encuentran sobradamente cubiertas tal y como

al próximo mes de febrero como se lo he dicho y estoy seguro de que la generosidad de los parlamentarios en relación con la donación de sangre será la misma en febrero que en diciembre y estoy seguro también de que pese a los excesos de navidad la sangre tendrá tan buena calidad en febrero como en diciembre

baieztatzen dituzte el grupo popular a lo largo de las diferentes legislaturas ha planteado

en euskadi en concreto las ayudas sociales y la gestión de lanbide servicio vasco de empleo

con los diferentes datos oficiales que está remitiendo el departamento de empleo y asuntos sociales a raíz de diversas preguntas planteadas por el partido popular

del señor consejero en la información que está proporcionando información sobre lanbide y en concreto sobre la empleabilidad de los perceptores de la renta de garantía de ingresos y también en relación a declaraciones que está realizando el propio consejero el señor aburto sobre datos

en el fraude en las ayudas sociales en sus distintos conceptos no se está dando respuesta a lo que se pregunta se están ocultando datos e información

de fraude e irregularidades ez da erantzuten galdetzen denari eta

empleabilidad de los perceptores de la rgi respecto a las personas que han firmado un contrato de trabajo desde que lanbide ha asumido la gestión en estas prestaciones económicas se nos ha dado la cifra de veinticinco mil seiscientos uno personas pero cuando se le pregunta

en relación al medio de búsqueda del contrato y la duración se responde lo siguiente

canal de acceso a los contratos cómo es posible señor consejero que usted diga ahora esto que no dispone de esta información que no tiene información fiable cuando en otra pregunta se afirmó que la intermediación de lanbide en todos los contratos

cómo es posible que antes nos pudiera dar esta información y que ahora no nos haya podido esa información porque no es fiable

la respuesta correspondiente en consecuencia estamos viendo que no se responden a las cuestiones concretas que se están formulando en otra pregunta también

territorio histórico de álava no aparece aparece como otro municipio espero que también nos lo pueda aclarar

y se reproduce la pregunta que hemos preguntado no es la pregunta que ha preguntado el partido popular por otra parte nos llama poderosamente la atención que usted cuando habla de fraude o irregularidades no se ciñe al contenido estricto de los datos que usted ha respondido de forma oficial en este parlamento

de fraude y de irregularidades de forma sesgada e interesada sailburuak errealitatea estali nahi du bere

de falsear y ocultar la realidad para tapar el fracaso de su gestión en lanbide no está siendo transparente al no dar la información que

interesada sesgada y partidista el señor consejero quiere disfrazar la realidad para tapar su ineficiente gestión que pone de manifiesto los datos

sesenta y cinco mil perceptores en este momento más sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis perceptores

millónes de euros de cobros indebidos sesenta y nueve millónes de euros sin recuperar según las respuestas por usted proporcionadas veinte coma nueve millónes de euros en el fraude e irregularidades

de las que se esperaba recuperar dos millónes de euros de los que se han recuperado solo medio millón

cartas para sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres perceptores

asegurar el acceso a las prestaciones y el cumplimiento de los plazos de resolución

pero a tenor de los datos no se están resolviendo de forma adecuada o

absolutamente inadecuada usted está más preocupado en generar confusión que en resolver los problemas reales que en estos momentos presenta lanbide usted ya ha reconocido que dos mil suspensiones al mes por irregularidades

es decir existe fraude picaresca y abusos y que hay revisiones un cuatro por ciento de las revisiones del año dos mil doce han acabado

helburuak bete ditzala no se están

para que lanbide funcione correctamente de acuerdo a los fines y objetivos que tiene atribuidos no se están cumpliendo los objetivos de empleabilidad ni de lejos señor consejero

razón de ser le recuerdo la cifra dos coma uno por ciento parlamentaria muy lejos de las cifras de otras comunidades o una cifra más baja que la presentada antes por el propio el sistema tiene que tener puerta de entrada pero puerta de salida señor consejero y existe por lo tanto una necesidad imperiosa de reorientar el modelo de gestión de lanbide hacia el sistema de empleo por no hablar de la reorganización pendiente de lanbide no conocemos nada en relación a la rpt está sin aprobar la rpt

para que lanbide desarrollara sus funciones y cumpliera sus objetivos no sé a qué esperan señor consejero bere sarrera

demostratzen du su actitud demuestra una clara huída hacia adelante señor consejero empeñado en minimizar los datos de fraude y abusos que usted mismo ha remitido a esta cámara

corregir las deficiencias que presenta el sistema errealitateari bizkarra ematen ari da consejero está dando la espalda a la realidad mirando hacia otro lado es que usted

controles que no es el momento de modificar la normativa vigente que no es el momento de abrir nuevos debates que las irregularidades en la percepción de las ayudas no alcanza niveles preocupantes usted está dando a la realidad de la calle y mirando

el sesenta y ocho por ciento de las personas encuestadas consideran que hay que modificar el sistema de protección

la espalda a la realidad la espalda a todos esos vascos que creemos que hay que abogar realmente porque el sistema sea justo

sino de europa y eso es legitimar el sistema señor consejero abogar realmente porque sea justo y solidario y no mirar otro lado cuando tenemos la realidad de los datos que usted mismo ha proporcionado cuando tenemos la realidad de la calle que claramente quiere que se modifique el sistema de ayudas sociales porque todos creemos y queremos que sea más justo y solidario y que realmente en el sistema estén los que tienen que estar y las personas que realmente necesitan ayudas y que realmente esas personas que están estén

estrictamente necesario pero que esas personas puedan tener una oportunidad al mercado laboral que es lo que en absoluto está cumpliendo lanbide cuando es uno de sus objetivos principales en definitiva una vez más se pone de manifiesto la incapacidad su incapacidad señor consejero para gestionar de forma eficaz lanbide la única solución que se le ha ocurrido ha sido la de establecer anunciar un recargo impositivo un impuesto específico para costear los servicios sociales plantea nuevos impuestos sí señor consejero lo dijo él y usted no se ha retratado de esas palabras

y quiere trasladar su responsabilidad la suya porque es la suya a los ciudadanos como si ya no les hubiéramos pedido suficientes sacrificios

realmente generando desconfianza en los ciudadanos en muchos ciudadanos en el sistema en vez de promover que sería su responsabilidad el respaldo y la defensa de un sistema

esto es legitimar el sistema garantizar que funcione bien que sea eficiente y sea justo y solidario y cumpla sus objetivos por eso le formulamos esta interpelación si usted señor consejero va a seguir ocultando la realidad de los datos que ponen claramente de manifiesto su ineficaz

si me permite le voy a pedir un favor señora garrido lo he hecho antes con el señor pastor

deje de falsear la realidad jamás jamás nunca si lo entiende mejor nunca he dicho

el sistema de protección social con los impuestos nunca y usted lo sabe pero le interesa manipular la realidad

una flagrante manipulación de la realidad quisiera señalar también que ninguna de las afirmaciones en la justificación de la interpelación resulta cierta que no se da respuesta a las cuestiones planteadas en relación a la empleabilidad de las personas

que mis declaraciones públicas no son coincidentes con los datos que el departamento proporciona y que por lo tanto no somos transparentes y sembramos confusión lo ha dicho usted ahora mismo en la tribuna

que han dado sobre la materia en primer lugar desde el uno de septiembre por ceñirnos solamente al actual periodo de sesiones periodo en el que parecen que han descubierto el filón

han sido dieciséis solicitudes de información que en conjunto contenían seiscientos cincuenta y dos preguntas

de nueve preguntas por día laborable más de nueve preguntas por día laborable en respuesta a estas preguntas hemos aportado treinta y siete mil ochocientos treinta y seis datos

de nuestras bases de datos datos objetivos señora garrido en todas las ocasiones en todas y cada una de ellas hemos aportado toda

aquella que entendíamos que se nos requería porque en más de una ocasión ha resultado difícil saber exactamente qué es lo que ustedes nos demandaban por ejemplo con respecto a perceptores no nacidos en españa ni nacionalizados ni pensionistas

del resultado de la pregunta tres cuántas personas integran en total las unidades de convivencia de las que forman parte además de la cifra global anterior cuántos titulares se corresponden

diferenciando en este caso los monoparentales de las parejas y cuántos de tres o de más miembros

hogares como unidades de convivencia pero en un hogar puede haber como usted sabe hasta dos unidades de convivencia a qué nos referimos con pareja

dos perceptores en una misma vivienda es decir nos hemos visto en ocasiones obligados a interpretar lo hemos hecho con la mejor voluntad de ahí

se ha podido trasladar algún error si ha sido así no tenemos problema en disculparnos reconocerlo y corregirlo

de los que lanbide no dispone eso ocurre por tres causas

o bien los datos aunque los usa lanbide no son de su propiedad y por lo tanto no puede facilitarlos o bien el cruce de datos que se solicita no es posible el primer caso cuando se nos pregunta sobre la duración de los contratos laborales

no podemos contestar porque no disponemos de ese dato simple y llanamente no disponemos de ese dato

cuándo inicia un contrato de trabajo pero no cuando cesa entre otras cosas porque no siempre solicitan de nuevo una rgi o su registro en lanbide puede pasar a otro trabajo

quién sabe y puede dar respuesta a cuestión quien lo sabe es la seguridad social

como por ejemplo los referidos al tipo de contrato o trabajo a tiempo parcial grupo de cotización no podemos facilitarlos porque no estamos autorizados podemos acceder a ella

propiedad y finalmente en el tercer caso y por la razón expuesta anteriormente

tenemos el mismo impedimento en relación a mis declaraciones siempre procuramos en el departamento que nuestras declaraciones sean coincidentes con la realidad que expresan los datos nosotros no intentamos retorcer la realidad de los datos para que expresen lo que queremos

hacía referencia en una respuesta que alguien calificó en una noticia como fraude y que ustedes esgrimieron durante días

con un único objetivo meterse conmigo yo no hago campaña electoral otros

estas son señora garrido las respuestas dígame usted dígame usted dónde ha dicho el departamento que hay veinte millónes de fraude

donde la pregunta sexta de la serie decía qué cantidad concreta de cobros indebidos corresponde a fraude de los perceptores y qué cantidad a ineficiencias en la gestión de lanbide ustedes mismos en la pregunta diferencian fraude de ineficacia pero luego en la respuesta no les interesa hacer la diferencia

y respondimos así ocultación de datos y actitudes fraudulentas fraudulentas fraude señora garrido directamente relacionado

y el resto no acredita situaciones económicas no aplica la prestación

irregularidades en definitiva administrativas la suma hace veinte millónes

los tres coma ocho millónes aquellos que hacen referencia a la intención de engañar

no consideramos como fraude el resto sino como ineficiencia puesto que estas personas comunicaron con transparencia los datos que nos llevaron a determinar indebidamente percibida y por lo tanto no hay intención fraudulenta alguien hizo la suma veinte millónes la calificó como fraude la publicó como fraude del conjunto el pp la puso en nuestra boca en nuestros papeles y

seguramente hasta que ustedes quieran ni este consejero ni este departamento han tratado de ocultar

lanbide no ha hecho más que aplicar la legalidad unas normas y criterios aprobados

con su voto se lo recuerdo así que si consideran que el sistema es un coladero como alguno ha dicho aplíquense la parte de responsabilidad que les corresponde yo no considero que el sistema es un coladero si lo que quieren es criticar

háganlo pero no conviertan para ello en defraudadores a miles y miles

ni traten de echar del sistema a miles y miles de personas que no tienen ningún otro recurso si lo que interesa es meterse conmigo háganlo

no metan en un saco de fraude generalizado al conjunto de los perceptores y aclaren de una santa vez si lo que quieren es modificar la ley

o como usted ha dicho hoy para determinar por cuanto plazo tienen que percibir las ayudas o si lo que quieren es mejorar

yo quiero mejorar el sistema y para eso me van a encontrar a su lado y finalmente en relación a la confusión han sido ustedes quienes han creado confusión la han creado tratando de encontrar en sus cientos de preguntas un dato

para encontrar un dato que pueda ser achacable un cruce una respuesta que sostuviera sus discursos públicos

a esa ocultación o supuesta ocultación de datos hay un error efectivamente en la documentación

usted ha hecho una pregunta y se le va a remitir la respuesta el error es un error sencillo es un error de maquetación

y además es fácilmente contrastable porque como usted mismo reconoce en el primero de los datos aparecen los tres territorios y luego aparece otro municipio desaparece una fila y se corre la lista pero es que además si hubiera habido una mínima voluntad por su parte se podía haber sacado el dato porque si a los totales le quitamos

una simple resta y porque además el ochenta por ciento de araba que es gasteiz

en todos y cada uno de los cuadros que les hemos dado nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna

reconoce que ha habido un error y como hemos reformulado la pregunta pues esperemos que ahí se pueda subsanar pero entiendo que cuando las preguntas y las respuestas mejor dicho como llevan su firma son

un error tan significativo como el que he señalado que en dos preguntas

se hubieran percatado ustedes si la hubieran repasado debidamente antes de remitirla

a las numerosas preguntas peticiones de información que está realizando este grupo que por cierto no son de ahora

y muchas se han reproducido ahora para hacer un seguimiento de la gestión

ni ha arbitrado medidas concretas para corregir esa deficiente gestión en lanbide que ya veíamos desde el principio de la legislatura y que también tendrán su responsabilidad en la misma quienes tuvieron responsabilidades de gobierno

se produjo la transferencia de las políticas activas de empleo y la gestión la asunción de lanbide

a esas respuestas estamos conociendo esa realidad y que se corrobora día a día la deficiente gestión de lanbide y sobre todo se corrobora

mira para otro lado y da la espalda a una realidad

de protección que no era el momento de modificar nada cuando ahora los ciudadanos nos está diciendo un sesenta y ocho por ciento que hay que modificar este sistema

aquí nadie quiere criminalizar la pobreza como usted también en sus sucesivas declaraciones ya no sé si tanto como consejero sino como candidato a la alcaldía

cuestiones está realizando no se trata de eso señor consejero se trata

y más solidario y arbitrar las medidas para ello

arbitrando esos mecanismos cuando tenemos a día de hoy una rpt

sin aprobar cuando tenemos una cifra de intermediación de un dos coma uno por ciento por cierto es que no entiendo cómo el veintisiete de mayo se nos decía

era de un dos coma uno por ciento y ahora nos dice usted de que no dispone información fiable relativa a la duración de los contratos

cuando en mayo sí la tenía señor consejero y nos la proporcionó

esto no es serio desde luego esto significa que no hay transparencia a la hora de ofrecer los datos por parte de su departamento

lo que pueden ser ineficiencias que es uno de los conceptos que puede estar en la cantidad también global de cobros indebidos y por eso queríamos saber porque nos llamó mucho la atención que haya ochenta y seis coma siete millónes de euros de cobros indebidos de los cuales todavía no se han recuperado sesenta y seis queríamos saber precisamente cobros indebidos o pagos indebidos porque si usted reconoce que muchos de ellos

y nos interesaba conocer la cifra concreta en esa cuantía global de irregularidades y fraude y usted nos habla de ocultación de datos y de actuaciones fraudulentas tres coma ocho

es una irregularidad señor consejero está dentro de las obligaciones tasadas en el artículo diecinueve de la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social es que no aplican la prestación a la finalidad o no administrar responsablemente los recursos es una irregularidad señor consejero

o no comunicar en el plazo establecido los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación suspensión o extinción del derecho de la prestación es una irregularidad señor consejero

del fraude de muchas instituciones de ayuntamientos de otras instituciones y estos supuestos están contemplados como supuestos de fraude

no trate de ocultar la realidad que tiene usted en el departamento y en lanbide

o no comunicar o no comunicar el plazo establecido es claramente una irregularidad
un abuso o un fraude llámalo como quieras eskerrik asko garrido andrea aburto jauna zurea da hitza

error significativo le he dicho que los datos estaban

con una simple resta señora garrido eso es significativo

en una hayamos cometido un error se nos puede tachar de falta de transparencia de verdad cree usted eso

le voy a hacer una pregunta señora garrido quién está aflorando la realidad de los pagos cobros indebidos

quién está poniendo los sistemas para que afloren señora garrido incluso los del dos mil doce señora garrido

quién lo está haciendo quién está estableciendo los mecanismos para que eso aflore y quién haciendo lo posible para que eso revierta al erario público

se habla también de nuestra deficiente gestión eso es algo evidentemente opinable le agradezco de todas formas que usted misma reconozca

es bueno sobre todo para las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos

el suyo y el mío debiera ser el de seguir mejorando yo así lo manifiesto pero no cuenten conmigo si lo que quieren de verdad es modificar

intentar que menos personas entren al sistema o que

sea por un periodo determinado de tiempo como ocurre

mire lo tienen muy fácil no me acusen a mí de mantener intacta la ley no me acusen a mí yo no tengo nada que ver con la ley yo soy el ejecutivo en este caso

tengan la valentía de presentar en esta cámara una proposición de ley y no recurran a argucias externas para que sean otros quienes lo hagan usted sabe qué es lo que han hecho usted lo sabe señora garrido esta cámara se ha pronunciado

y este consejero evidentemente será fiel a lo que esta cámara decida ha hablado también de criminalizar

quien ha dicho que determinados colectivos viven de las ayudas sociales y que les ha puesto en el centro del objetivo no he sido yo señora garrido

usted sabe perfectamente quién ha sido respecto a la cifra de los cobros indebidos la cifra la dije yo en una comisión parlamentaria fui yo quien la afloré señora garrido

ningún problema en reconocer aquello que está mal y que hay que corregir mire yo no voy a discutir con usted si la irregularidad es un fraude o no lo es irregularidades administrativas hay muchas y no todas ellas son fraude en todo caso será una visión o una opinión diferente pero

no nos acuse de eso esa ética indispensable para que la política discurra por otros derroteros creo que debiera residir también en este tipo de debates irregularidad para mí

en todo caso en las manifestaciones que nosotros hacemos en la pregunta

y son ustedes quienes suman todo y convierten los veinte millónes en fraude son ustedes no he sido yo luego por lo tanto no me acusen a mí de esa realidad

hoy podría aportar algunos datos más el número de perceptores extranjeros

en este caso cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho se corresponden con personas que no son pensionistas y de esos los extranjeros diecisiete mil setecientos noventa y tres de fuera del estado marruecos es la

t así podríamos seguir aportando datos y datos y más datos y que están disponibles para el partido popular y para el resto del arco parlamentario a mí me gustaría que fuera con la finalidad de mejorar nuestro sistema de protección

es ahí y después de hablar con los agentes implicados en concreto con ehlabe con la federación de centros especiales de empleo

hasta entonces debemos sujetarnos a la normativa que existe en estos momentos en función de esa normativa lanbide subvenciona los contratos con el cincuenta por ciento del salario mínimo interprofesional los salarios están fijados de forma mayoritaria por los convenios colectivos son los convenios colectivos fijan las condiciones de cada una de esas empresas y por lo tanto las condiciones de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de los centros especiales de empleo

es cierto que en estos momentos en algunos centros especiales de empleo hay
ocasiones mesedez isiltasuna hay ocasiones en las que las personas con discapacidad que acuden a ellos

inferior al fijado por el salario interprofesional y así está reconocido en el propio convenio colectivo firmado por los agentes sociales

a la actividad hay personas que en función de sus circunstancias solo desarrollan jornadas a tiempo parcial ajustándose su salario a ese tiempo hay otras que aún haciendo jornadas completas como usted ha reconocido

y lo hacen porque en función de sus capacidades ocupan lo que se denominan plazas de bajo rendimiento plazas y situaciones contempladas

la subvención de lanbide por estos trabajadores y trabajadoras está también disminuida en los porcentajes equivalentes finalmente si algún centro especial no cumpliera con la legalidad actuaría la inspección de trabajo como lo haría en cualquier otra situación creo por una parte

es un modelo es una referencia a nivel del estado la convivencia entre centros especiales de empleo y centros ocupacionales también y creo y creo que la jubilación

es un reto pendiente a abordar porque la jubilación de las personas con discapacidad parece que tiene unos condicionantes diferentes a la jubilación de las personas

la pregunta que le formulamos en el día de hoy tiene que ver con un acuerdo que se adoptó en esta cámara el veintiocho de noviembre de dos mil trece en cuyo párrafo segundo decía que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que concluya la relación de puestos de trabajo en lanbide

respetando en todo caso las condiciones laborales de los trabajadores del servicio vasco de empleo que hubieran alcanzado por su trayectoria laboral en la administración al mismo tiempo el real decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno barra dos mil diez sobre traspaso de funciones y servicios a la comunidad del país vasco en materia de ejecución de legislación laboral en el ámbito del trabajo del empleo y la formación profesional en el apartado f del anexo dice que ese traspaso se hará en las mismas circunstancias que figuran en el expediente personal laboral o los funcionarios de lo que se trate por lo tanto la pregunta

de lanbide el apartado dos de este acuerdo parlamentario en el bien entendido de que respetar este acuerdo no supondrá en ningún caso

legebiltzarkideok sailburu señor itxaso tal y como he manifestado en varias ocasiones en esta cámara lanbide debería haberse dotado de una rpt hace mucho tiempo antes de que este gobierno incluso asumiera su gestión

una relación de puestos de trabajo que dote de mayor eficacia el organismo ahora lastrado por la imposibilidad de hacer sustituciones cubrir bajas o jubilaciones

nuestra tarea ha consistido en diseñar un nuevo modelo territorial y funcional que nos asegure unos niveles de intermediación y de gestión mejores que resulten óptimos

atendiendo a las necesidades del organismo a partir de ahí quisiera también recordarle

a quien le ha correspondido la tarea efectiva de desarrollar el proceso negociador atendiendo la normativa actualmente vigente y a los acuerdos entre gobierno y sindicatos

de parte del personal para políticas activas de empleo eskerrik asko aburto jauna

bueno señor consejero empieza haciendo en su manifestación una declaración que

rememorar cuál fue la génesis de lanbide y el papel que llevó a cabo su partido estando en la oposición en aquel entonces y que descansa esto en función pública sí

porque usted como consejero de empleo y máximo responsable de lanbide

creo que a usted le tiene que importar le tiene que importar y le tendrá que importar que esa rpt que no es el objeto de esta

hoy de lo que se trata es de saber si va haber un escrupuloso respeto a las condiciones laborales o funcionariales del personal transferido y si va a ser en idénticas condiciones de tratamiento con independencia de si su procedencia es del departamento

le pregunto en el día de hoy que la rpt es muy importante y que tiene una trascendencia

eso está fuera de discusión lo que en estos momentos a nosotros nos preocupa y es una preocupación además que se nos hace llegar por colectivos de trabajadores concernidos si se van a respetar esas condiciones laborales alcanzadas bien por su expediente laboral o incluso en algunos casos mediante sentencias firmes que

pasando a fijos y en otros casos no se está haciendo eso entonces ante esta desigual forma de tratamiento por lo menos en principio aparente o de la que tenemos alguna noticia es sobre lo que preguntamos es lo que queremos saber lo que queremos saber es

porque el propio convenio colectivo de los colectivos de trabajadores de la comunidad autónoma del país vasco en el artículo siete dice que son irrenunciables los derechos que hayan alcanzado los trabajadores que no valen resoluciones o cláusulas que menoscaben sus condiciones más beneficiosas por lo tanto

voluntariamente por el gobierno obviamente la rpt va a tener problemas de aprobación y eventualmente la convocatoria posterior de oferta pública de empleo

taxativamente se van a respetar esas condiciones en igualdad de tratamiento según la procedencia y en función de lo que es el expediente personal de cada uno

sí señor itxaso me preocupa y mucho creo que es un instrumento

y espero que en los comienzos del año próximo podamos disponer de ese instrumento que sin duda va a mejorar nuestra gestión

las condiciones laborales respetando las condiciones laborales de los trabajadores del servicio

en la administración dicho respeto a las condiciones laborales se manifiesta en relación

tanto el estatuto básico de empleado público como la ley de función pública viene a decir que en los procesos de integración de los funcionarios transferidos

del cuerpo o escala de procedencia así como los derechos económicos inherentes a esa posición se respeta como no puede ser de otra manera y luego la ley de función pública añade que se integrarán en los cuerpos y escalas de su administración de destino conforme a ese cuerpo de procedencia primera cuestión segunda cuestión respeto de las retribuciones consolidadas

tenía reconocidas en el momento de su integración en dicho organismo autónomo

hablaba sobre los complementos de productividad y decía ese acuerdo

complementos de productividad que traían de la administración de origen respecto

el proyecto de rpt respeta el nivel de grado consolidado ha sido un elemento a considerar además en la asignación de los distintos niveles retributivos y por último señor itxaso mantenimiento hasta la aprobación de la rpt de las retribuciones establecidas por acuerdo de consejo de gobierno

sabe usted que existe ese acuerdo y que dicho acuerdo tiene por objeto la revisión con carácter provisional de las retribuciones del personal funcionario y laboral transferido en tanto no sea objeto de aprobación la relación de puestos de trabajo de lanbide la diferencia de retribuciones seguirá abonándose como un complemento personal transitorio

tendrán carácter retroactivo al uno de enero de dos mil once por lo tanto hay unas retribuciones provisionales que son provisionales que

en la rpt cuál es la retribución de ese puesto finalmente

al uno de enero de dos mil once hasta la fecha se está abonando con normalidad el referido complemento personal transitorio eskerrik asko aburto jauna

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos señora consejera las normas éticas y de conducta deben ser una máxima para fomentar la integridad y la actuación eficiente en la gestión pública así como una necesidad para preservar y reforzar la confianza ciudadana en sus propias instituciones

la imparcialidad la transparencia la objetividad o la ejemplaridad

a la gestión de cualquier responsable público supongo que en eso estará de acuerdo conmigo

la imparcialidad y la objetividad vienen determinadas por la toma de decisiones basadas en criterios alejados de la arbitrariedad y de la discrecionalidad la eficiencia debe perseguir un uso adecuado de los recursos públicos que eviten despilfarros o pérdidas como consecuencia de decisiones inadecuadas la transparencia y la ejemplaridad

toda la información en nuestro poder y colaboremos en el esclarecimiento de cualquier sospecha que penda sobre nuestra gestión todos estos planteamientos que desde el grupo popular compartimos en su totalidad vienen recogidos en el código ético aprobado por su gobierno

hemos hablado del caso del polideportivo de pinosolo en leioa ejemplo a nuestro juicio de una gestión de inicio a fin contraria al espíritu y a la letra de su código ético su gobierno como usted ha dicho forma parte del consorcio de transportes de bizkaia

cuyo director gerente en la actualidad el señor arruabarrena fue el anterior alcalde de leioa y el máximo responsable de la pésima gestión política y sobre todo económica

pero al margen de estas ustedes aprobaron como he dicho anteriormente un código ético que exige una serie de condiciones y requisitos en el ámbito de la gestión pública y si algo ha quedado acreditado es que la gestión política del señor arruabarrena según información proporcionada por el propio consistorio

pérdida que se puede ver aumentada por las indemnizaciones teniendo en cuenta todo esto considera usted que el señor arruabarrena cumple con los criterios establecidos en el código ético aprobado por su gobierno y debe continuar

con el mismo tema por supuesto que estoy de acuerdo con esos principios generales de hecho como no puede ser de otra manera yo también he firmado ese código ético e intentamos cumplirlo no solo intentamos sino que lo cumplimos en nuestra gestión todos los cargos todos los altos cargos del gobierno vasco en cuanto a si son decisiones inadecuadas o no

del código ético pues mire lo he dicho antes también contestando a otra pregunta sobre este mismo punto

en juez ni en comisión de ética unipersonal tampoco hay unos documentos son públicos están aprobados se aplican a los altos cargos del gobierno vasco y también

evalúa valora después de hacer unos informes y después de analizar todas las cuestiones y toda la documentación por tanto no seré yo la que

con esa facultad eskerrik asko

porque lo que ha quedado claro es que esto su código ético para ustedes es papel mojado una simple declaración de intenciones y más valor que la de cumplir un mero trámite un buen ejemplo por tanto de propaganda

de ese código ético ese es el caso de pinosolo que ha estado absolutamente plagado de irregularidades no ha existido ejemplaridad señora

y no creo que su gestión sea seleccionada como un modelo a seguir por ningún responsable político

por su ausencia y ha estado marcada por la discrecionalidad y la arbitrariedad amenazas

publicaciones del proyecto ganador con un año de antelación a la licitación o pérdidas de dos millónes de euros en un polideportivo fantasma lamentamos su respuesta señora oregi ha tenido la oportunidad de ofrecer una imagen

pero ustedes anteponen la protección del propio aunque sea a costa del erario público al interés general subordinan

y se dedican a proteger a quienes con su gestión realizan un ejercicio

en definitiva una vez más y ya son muchas señora oregi siempre el partido

no sabía que era usted también presidenta y miembro colectivo o unipersonal del comité de ética y de tantas otras cosas tampoco sabía

unos mecanismos que los aplicamos y que los aplicamos todos con absoluto respeto a las leyes y a las normas eso también es parte del código ético el código ético también nos obliga a todos a los miembros del gobierno desde luego

pero este código ético nos obliga a nosotros a los miembros del gobierno a actuar bajo todos esos parámetros que usted nos ha recordado y así lo hacemos y este código ético es un código ético avanzado exigente que cumplimos y que respetamos

zuk esan duzun bezala honetan gaude campaña sísmica terrestre bid en el permiso de investigación de hidrocarburos géminis hori da izena hori da proiektua

hangoa da subdirección general de evaluación ambiental del ministerio órganos del departamento consultados tramite horretan bakarrik esan dizudana gurea eta